las últimas semanas hemos tenido la oportunidad de conocer el hecho de que varias familias vascas

por carta el reconocimiento del derecho a la exhumación de los restos de sus seres queridos

es un paso adelante muy importante que nosotros celebramos y no obstante

entender que todavía quedan incertidumbres por resolver dudas por aclarar y muchos pasos por dar un camino por recorrer

debe hacerse cuanto antes porque no podemos obviar que muchas de esas personas familiares tienen una edad avanzada y después de mucho tiempo esperando demasiado tiempo esperando

que hay que poner en valor y que nosotros desde nuestro grupo queremos poner en valor ya no les queda ni tiempo ni fuerzas para seguir

el gobierno vasco cuál es la relación del departamento tanto con el gobierno del estado como con las propias familias y de qué manera está trabajando el instituto vasco de la memoria gogora
para ayudar a que esas familias vean ejercidos sus derechos eskerrik asko eskerrik asko

y desde otros puntos de la península tres centenares de vascos fueron llevados sin identificar en el valle de los caídos hay más de treinta y tres mil restos humanos

no contó con el consentimiento de sus familias hamarkada asko igaro dira bi mila hogeian milaka familiak ezin izan dute

veintitres familias vascas han iniciado los trámites para solicitar la inhumación y recuperar los restos de los familiares llevados en los años cincuenta a cuelgamuros

a día de hoy sabemos que una veintena han obtenido el certificado de reconocimiento

de un total de cincuenta y cuatro solicitudes que han culminado el proceso y han obtenido el reconocimiento en todo el estado

y esta proporción nos da la medida del apoyo que han recibido por parte del gobierno vasco para realizar las gestiones primero para asegurar que su familiar estaba inhumado en el valle y luego para solicitar su exhumación en estos momentos sabemos que la secretaría de estado de memoria histórica está diseñando la inminente

equipos técnicos estudiarán la viabilidad de la inhumación de cada uno de los cincuenta y cuatro restos humanos solicitados sabemos también ya dónde están ubicados los veinte casos vascos

y desde gogora seguimos en permanente contacto con las familias esta misma semana hemos tenido una reunión con todas estas familias les pude ver esperanzadas quieren terminar con tanta incertidumbre entendí sus sentimientos hobeto ulertu nuen haiek berreskuratzeko irrika urte hauetan guztietan

diegu prozesua amaitu arte su anhelo es un deber institucional y así lo asume el gobierno vasco en su integridad acompañaremos a todas las familias

trataremos de reconstruir también las historias de aquellos jóvenes se vieron truncados

por aquella guerra injusta el siguiente paso será la recogida de las muestras de adn de los familiares más cercanos y apropiadas para los cotejos genéticos

toda esta información ha sido también compartida con el consejo de dirección de gogora sabemos que no va a ser fácil

el proceso es muy complejo pero tenemos que tener esperanza

o debido a la imposibilidad de la identificación no obstante merece la pena el gobierno vasco a través de gogora ha estado

y no se trata de reabrir heridas tratamos de restaurar la dignidad eskerrik asko artolazabal andrea gai zerrendako bigarren puntua

birusari aurrea hartzea ez dugula lortu el índice de positividad está entre el cinco coma dos y el siete por ciento en un total de veinte días

osasuna indartu egin behar da porque no basta con llamar a la responsabilidad ciudadana que la inmensa mayoría ha demostrado con creces

no puede ser que los datos que europa considera de extremo riesgo aquí los demos casi por buenos

sin criterios claros o con criterios que no conocemos ni establecidos de antemano esto no puede ser

ni tampoco puede depender del calendario ni de las navidades ni de la semana santa ni de las vacaciones

le propongo que adopten los criterios del centro europeo del control de enfermedades en cuanto a la definición de caso

mejora pero debemos mantener la responsabilidad individual y colectiva el tercer

señala literalmente que las medidas adoptadas desde mediados de octubre han tenido como efecto

la situación es de tendencia a la baja en la tasa de incidencia acumulada con previsión de que esta incidencia y de que esta tendencia se mantenga de forma más amortiguada ya sabemos que si fuera por ustedes estaríamos seguiríamos desde marzo en confinamiento domiciliario total

la pregunta es qué puedo aportar cómo puedo mejorar esta situación ya sabemos que para ustedes también la culpa de que exista una pandemia es del gobierno vasco y del lehendakari en todo caso contamos contamos con los cauces para

actuemos en positivo en lugar de promover discusiones estériles que no aportan nada

mugikortasunerako ezinbestekoa den proiektu bat es un proyecto estratégico para gipuzkoa el metro de donostialdea como en su origen por el consejero arriola un proyecto de indudables beneficios sociales y rentabilidad tanto social también como económica y en otros aspectos rentabilidad

porque es un medio que es sostenible también en cuanto a parámetros económicos de costes beneficios tiene rentabilidad urbanística porque va a posibilitar la regeneración de muchos espacios y que los peatones ganen

es sostenible en tanto en cuanto reducirá el ruido en nuestras calles reducirá también la emisión de ce o dos y posibilitará que menos vehículos transiten por las calles de donostialdea es un medio eficiente y fiable por su rapidez y por su puntualidad

accesible porque aquellas personas que tienen determinadas dificultades podrán tener una accesibilidad plena a un medio de transporte que en otros medios

seguro porque es el medio que menos accidentes tiene y también es el medio más seguro porque posibilita un tránsito nocturno de los usuarios

seguridad es un medio flexible porque permite modular horarios y frecuencias es un medio que va a permitir adaptar también la movilidad y un medio de transporte público a los eventos que se realicen en la capital del territorio es un medio que tiene indudable rentabilidad social para trabajadores y trabajadoras y para estudiantes a sus centros de trabajo o a la universidad a realizar sus estudios correspondientes es un medio que afectará a la movilidad de más del sesenta por ciento

como todo proyecto de envergadura es un proyecto que evidentemente también representa dificultades las hemos tenido durante el desarrollo de las obras

respondiendo directamente a su pregunta puedo decirle que ayer mismo se cerró un acuerdo entre ets y la unión temporal de empresas miraconcha easo para la rescisión del contrato

del topo de donostia san sebastián esta medida como he tenido ocasión de explicar otras veces en esta cámara venía obligada legalmente

entre las futuras estaciones de easo y miraconcha

y entrañaban por otro lado un incremento sustancial del presupuesto es por ello que la cuestión

al plantearse esta cuestión concluye que la ley de contratos del sector público

teniendo en cuenta su entidad y su coste y añade además

este informe que lo procedente es resolver el contrato

ejecutarse como consecuencia de las incidencias geotécnicas detectadas a partir del día cuatro de junio

y la ute se ha alcanzado un acuerdo para la resolución del contrato en la parte de la obra afectada por dichos problemas geológicos

en dos ámbitos muy concretos el mantenimiento y seguridad de las galerías ya excavadas y el desarrollo de los trabajos en superficie

a la ciudadanía según este acuerdo que contempla también el abono

y sin perjuicio de que la ute pueda realizar una reclamación patrimonial sobre algún aspecto las obras ya ejecutadas en base al contrato original y los modificados aprobados a fecha treinta y uno de noviembre se valoran en treinta y uno coma ocho millónes de euros y los trabajos que va a seguir realizando la contrata se estiman en tres coma seis millónes de euros en total treinta y cinco millónes trescientos ochenta y tres mil novecientos sesenta euros

básicamente en el revestimiento estructural con hormigón de las cavidades ya excavadas

y además asegurar la conclusión en el plazo previsto de las obras

que afectan al tráfico rodado y peatonal además la contrata seguirá con la ejecución de los trabajos previstos en los dos expedientes de emergencia

en paralelo se ha estado elaborando un nuevo proyecto reformado que define los nuevos trabajos que es preciso acometer en el tramo para solventar los problemas geológicos

antes de que termine este mes de forma que el proyecto pueda adjudicarse a finales

en estos momentos se están ultimando los detalles de este proyecto y la cuantía por la que saldrá a licitación pero quiero recordar que el tramo miraconcha easo fue presupuestado

ets en setenta y uno millónes de euros que sumados a su precio de adjudicación

y las dos actuaciones de emergencia aprobadas durante su ejecución el proyecto tenía ya un coste comprometido

millónes de euros eskerrik asko

un ejercicio de memoria y poner en común además con el resto de los grupos parlamentarios y también con la ciudadanía en general un juego del gato y el ratón al que nos hemos visto sometidos por parte

llevamos es verdad desde el día nueve de octubre haciendo preguntas por escrito

en aquel acuerdo lo primero que hicimos fue preguntar por las políticas de prevención de las violencias machistas

evolución de las mismas durante la pandemia fueron once preguntas de ellas diez de las respuestas comenzaban de la misma manera

va a resultar difícil y casi la mitad terminaban con este otro eufemismo

que resultaba imposible por ejemplo formar al cuerpo de funcionarios en prevención de violencias machistas aunque fuera de manera telemática en otras ocasiones hemos hecho otras preguntas y se nos han dado respuestas incompletas y hemos tenido que pedir amparo a la mesa

para poder recibir una contestación digna y para saber por ejemplo finalmente que tan solo dos empresas se han beneficiado de los fondos ezten es verdad ayer no antes de ayer ayer

del acuerdo presupuestario es una respuesta que contiene

y que lógicamente no hemos podido estudiar a fondo aunque sí que en un primer vistazo

que se puede concluir que existen incumplimientos y desvíos de fondos y también algún cumplimiento

de octubre el veintitrés de octubre venció el plazo y se nos pidió una prórroga esta prórroga el plazo de esta prórroga terminaba ayer y fue ayer por la tarde cuando recibimos la contestación esto no es serio

creemos que es insostenible el grado de oscurantismo y la falta de información de su gobierno

y lo vemos entre otras cosas en la demora para informarnos sobre el grado de incumplimiento del acuerdo las bases de un acuerdo se sustentan en el respeto y en la colaboración mutua

colaboración con subordinación y acuerdo con cheque en blanco vamos a estudiar a fondo las respuestas no lo hemos hecho todavía vamos a estudiar a fondo y veremos

nos aportan en todo caso sí me gustaría decirle que resulta que nos ponen muy difícil con este proceder poder colaborar y llegar a acuerdos

como el actual aunque usted no participó en la votación de los presupuestos para este año resulta complicado ejecutar los presupuestos tal y como en diciembre del año pasado se presentaron y se aprobaron en todo caso el gobierno ha cumplido razonablemente los compromisos

renovación de las ayudas a los ayuntamientos para planes de sostenibilidad energética aumento de las dotaciones al consorcio haurreskolak y a los centros uned en euskadi ampliado el fondo de capital riesgo scene

en el ámbito medioambiental también hemos cumplido lo firmado esto es y reitero lo que en estas últimas horas se está insistiendo no se concederán más solicitudes de exploración de gas y se suprimirá la dotación presupuestaria

para nuevos proyectos de investigación y este compromiso está cumplido en la reunión que mantuvimos le mostré el documento de seguimiento del acuerdo y efectivamente quedan aspectos pendientes

y hemos tenido que reasignar partidas el carácter social de los presupuestos del año dos mil veinte se ha reforzado precisamente

esenciales de salud educación y protección social y esta prioridad social se va a reforzar en dos mil veintiuno reitero que hemos comprometido ante ustedes y públicamente dar continuidad a los compromisos adquiridos y su cumplimiento en dos mil veintiuno un año en el que esperemos baje la presión de la afección directa del coronavirus además los partidos a los que pertenecemos señora gorrotxategi han acercar posturas y alcanzar un amplio acuerdo transversal para la aprobación de los presupuestos del gobierno español para dos mil veintiuno

de las dificultades que vivimos exigen priorizar los acuerdos y aunar fuerzas superamos también el proceso para alcanzar el acuerdo en relación al ingreso mínimo vital

que está beneficiando a la sociedad vasca que el gobierno vasco está cumpliendo

es cierto que las cuentas públicas en euskadi están garantizados con la mayoría absoluta de los partidos que conforman el gobierno

hemos mostrado nuestra disposición a enriquecerlas con el concurso de la oposición esta es nuestra voluntad y usted la conoce de primera mano con respeto con diálogo

estoy convencido de que seremos capaces de pasar de la fase de escenificaciones de propuestas o de protestas a la más efectiva de la materialización de acuerdos eskerrik asko

en las últimas horas lehendakari se ha confirmado el contagio de su gobierno con el gobierno de su socio el señor sánchez el contagio de sus peores modos y maneras estoy hablando me estoy refiriendo a lo de la falsedad y errores en relación con la pandemia

una foto para tomar decisiones cara a la navidad pero ha resultado una foto movida una foto que pone en entredicho la credibilidad de su gobierno si el gobierno de su socio el señor sánchez miente en el número total de fallecidos en españa ayer mismo vimos como donde para sanchez uno

no existe en su gobierno nada más y nada menos nos da desviaciones del cincuenta por ciento en los ingresos hospitalarios por supuesto

asuma la responsabilidad política y yo le digo que no se pueden tratar a los enfermos como errores informáticos porque eso sería

y lo cierto es que la verdad presente sigue siendo dolorosa es verdad

la fotografía de hoy es semejante a la de cuando comenzamos a tomar medidas decía después de muchas semanas

y la consecuencia es la prolongación de medidas restrictivas de cuya necesidad no dudo pero que implican

en estas circunstancias la campaña de navidad estará a medio gas para el comercio y sin cenas sin barras con terrazas en invierno

se lo han dicho con claridad diferentes sectores y los hosteleros se han revelado contra el cierre de las barras

y se sienten señalados injustamente como responsables de la evolución de la pandemia

categóricamente el secretario general de los hosteleros guipuzcoanos ayer

le dijo si piensan que con este caramelo estamos contentos están equivocados no se puede ser más claro por tanto en nuestros sectores sociales y económicos

qué compromisos concretos se incorporarán en estos presupuestos y con qué sectores de actividad

de rescate de doscientos millónes para la hostelería que llevamos meses reclamando desde el partido popular y ciudadanos eskerrik asko iturgaiz jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

al intento de evitar cualquier ámbito de crispación utilizando la pandemia como excusa y yo lo voy a seguir defendiendo

el del partido popular ciudadanos apunta a una clara convergencia en el objetivo de sostener el empleo luchar contra la precariedad y la temporalidad apoyar a la empresa y las personas emprendedoras reactivar la economía y volver a situar la tasa de desempleo por debajo del diez por ciento

para ayudar en la economía siempre tendrá al partido popular

entre nosotros pero lehendakari yo creo que fuera de las diferencias políticas e ideológicas yo creo que hay que tomar decisiones

sería muy importante de verdad que rectifiquen en algunas cuestiones

por qué se tienen que cerrar los restaurantes y los bares a las ocho de la tarde siendo un agravio comparativo teniendo un agravio comparativo con los comercios o las grandes superficies que cierran a las nueve

por qué no pueden cerrar también esa hostelería a las nueve de la noche porque eso le ayudaría

eso es lo que le pedimos y le exigimos desde el partido popular y ciudadanos y que

es de racionalidad y en la racionalidad está también

con ese sector ese sector que lo está pasando mal que necesita también esa hora algunos dirán

lo están diciendo los propios hosteleros yo creo que

que de la misma manera que en el comercio nosotros vamos a pedir ayudas para los

en las que gobierna en todo caso voy a lo sustancial de lo que era la pregunta original porque no he encuentrado la pregunta original en lo que ha sido sus dos exposiciones para nada comparto con usted que los presupuestos son una excelente ocasión para ordenar prioridades y aplicar los recursos allí donde más falta hacen donde puedan salvar vidas y empleos aprovechando nuestra capacidad financiera fiscal de hecho los criterios para el presupuesto dos mil veintiuno

primero garantizar la estabilidad fiscal y la disposición de recursos extraordinarios ya acordados en la comisión mixta del concierto déficit del dos coma dos por ciento y deuda del dieciséis coma nueve por ciento y segundo incorporar las ayudas extraordinarias que a lo largo de dos mil veinte han supuesto y supondrán compromisos de gasto plurianual

en función de la evolución de la pandemia o de la situación económica algunas prioridades a mantener en el presupuesto dos mil veintiuno están fundamentadas en ayudas extraordinarias

como han sido y reitero lo expuesto en sesión anterior precisamente también en respuesta a usted por una parte recursos extraordinarios para el departamendo de salud y osakidetza

ciento siete millónes por otra parte ciento sesenta y seis millónes adicionales de ayuda para los sectores económicos más afectados por la crisis

a través de elkargi para las empresas hoy el importe

y doscientos sesenta y cuatro millónes están pendientes de adjudicación además

la mejora de las condiciones de estos prestamos a las empresas de un nuevo programa de apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas personas individuales empresarias o profesionales autónomos también ampliando

y también el plazo de reintegro el martes comprobará usted que contamos con un espacio cierto para el acuerdo porque vamos a mantener el plan de choque covid la línea de financiación para empresas los recursos extraordinarios para los servicios esenciales y el apoyo a los sectores económicos más afectados por la crisis las pequeñas y medianas empresas comercio hostelería

se aprobó crear una línea específica de apoyo financiero a determinados sectores más castigados como consecuencia de la pandemia

desde vox tenemos interés en saber su posición como lehendakari respecto a las nuevas directrices revisadas sobre la celebración de referendums el pasado siete de octubre del dos mil veinte en el consejo de elecciones democráticas en su hirurogeita bederatziava reunión y adoptados así mismo el día ocho y nueve de octubre
europea para la democracia a través del derecho es decir la comisión de venecia eskerrik asko eskerrik asko martínez andrea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señora martínez mire valoro que la comisión de venecia responde a lo que es una tendencia general en europa porque regiones
ciudades pueblos o naciones sin estado estamos demandando un mayor reconocimiento y participación

que permita un reparto de competencias y también de soberanía

son varias las ocasiones en las que les hemos escuchado a su partido hablar de la necesidad de un referéndum para solucionar la cuestión de la soberanía y la autodeterminación usted además fue la persona encargada de gestionar y mediar ante la crisis catalana de primeros de octubre del diecisiete con aquel plebiscito ilegal que lejos de solucionar nada

el citado acuerdo de la comisión de venecia apartado tres punto uno habla en concreto de la validez sustantiva de los textos sometidos a referéndum en ese sentido el documento dice

ni a las condiciones de pertenencia al consejo de europa los estados pueden añadir otras limitaciones como ve europa toma un claro partido por la constitución española y deja claro que todos los referéndums deben ceñirse a ese marco legal

son los estados los que deben marcar el ritmo no podemos ser europeos a tiempo parcial o lo que es peor no podemos ser europeos para unas cosas y no para otras

días antes del esperpento catalán usted dijo ese referéndum no tiene garantías pero puntualizó

el presente acuerdo sin embargo lo que certifica es la prioridad de la constitución en especial si hablamos de autodeterminación

la soberanía nacional reside en el pueblo español muchas veces hemos oído al pnv decir nos veremos en europa cuando ha habido roces con el gobierno de españa pues bien

entendemos en coherencia con su europeísmo que es de prever que renuncien a ese modelo de referéndums incompatibles con la constitución española

realmente lo harán o seguirán insistiendo en fórmulas no avaladas por europa

en aras de dar cobertura a proyectos profundamente antidemocráticos y contrarios al interés de los españoles han terminado por caer por su propio peso la democracia

precisamente la virtud del régimen democrático es el respeto a las instituciones y a los marcos legales establecidos como digo la comisión de venecia del consejo de europa

no permitidos por la constitución del país en el que se celebre dicho esto renunciarán a los referéndums como herramienta para dar cobertura a propuestas

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señora martínez ser europeos mire

con las y los embajadores europeos que he mantenido he recordado la necesidad de convocar la conferencia sobre el futuro de europa que sirva

para habilitar una auténtica gobernanza multinivel que cuente con las regiones o realidades nacionales muy especialmente con las que disponemos de competencias legislativas estamos planteando avanzar en un modelo capaz de unir elementos positivos de los modelos confederal y federal que limite la exclusividad del estado tanto en el ámbito interno como en el internacional

de su propia realidad plurinacional señora martínez y dar así cumplimiento a la propia constitución dar así cumplimiento a la propia constitución usted ha citado la constitución

reconocida expresamente en la disposición adicional primera la constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales

el tribunal constitucional ha ratificado la importancia y alcance de los derechos históricos a esta legitimidad se añade la disposición adicional única del estatuto

la aceptación del régimen de autonomía que establece el estatuto no implica renuncia del pueblo vasco a los derechos que como tal le hubieran podido corresponder en virtud de su historia

de acuerdo con lo que establezca el ordenamiento jurídico lo reconoce usted señora martínez esta legitimidad trae consigo dos consecuencias euskadi constituye de forma indubitada una entidad nacional propia y euskadi queda legitimada para acordar un pacto bilateral

en el que se establezcan y garanticen sus poderes y sus competencias así se definió como pacto por la representación política del estado al estatuto aprobado en referéndum en mil novecientos setenta y nueve e incumplido hasta hoy incumpliendo una ley orgánica y la propia constitución incumpliendo una ley orgánica e incumpliendo la propia constitución

y el reto es conseguir un consenso plural y sólido entorno a un gran proyecto de autogobierno un nuevo pacto político que sea expresión de nuestra realidad nacional propia singular y diferenciada señora martínez con la comisión de venecia el reto desde la responsabilidad pública es evitar cualquier forma de fractura social institucional o política desde el punto de vista democrático la responsabilidad es articular mecanismos consensuados para que las sociedades puedan expresar su voluntad sobre su futuro político

entiendo la unión europea como una oportunidad defiendo la necesidad de habilitar cauces legales para que las comunidades políticas que mediante decisión expresa y clara de sus instituciones parlamentarias de autogobierno

quieran consultar a la ciudadanía sobre su futuro puedan hacerlo ese es mi propósito ese es mi deseo creo que el de todas y todos debería ser el mismo eskerrik asko

contribuir al pleno desarrollo del derecho al empleo estable y de calidad así como favorecer la cohesión social a través de la gestión de las políticas de empleo lanbide a día de hoy no cumple ese objetivo en nuestra opinión desde que se realizó la transferencia de las políticas activas de empleo han sido muchos los problemas y las carencias en el modelo de atención

ha hecho que lanbide no pueda dedicarse al empleo las cosas hasta ahora

habría que cambiar ese modelo para potenciar lanbide y convertirlo en aquello para lo que realmente se creó para ser el sistema vasco de empleo para que juegue de verdad importante papel que le corresponde respecto al empleo

que hay que hacer cambios en lanbide algo que nosotros venimos reivindicando hace tiempo nos interesa mucho por lo tanto saber qué cambios consideran que hay que empezar

nos alegramos de que de la metodología que usted nos transmite hoy que van a utilizar y queremos además ser pacientes no queremos negarle a usted la posibilidad de cumplir

pero entienda nuestra preocupación nosotros seguimos preocupadas y preocupados viene motivada porque la pasada legislatura creemos que empezó igual

a proceder a la reforma y modernización del servicio público de empleo lanbide

un compromiso que desde luego en nuestra opinión no se cumplió

las cosas siguen igual nosotros le reclamamos que aborden de verdad y por fin el cambio que necesita lanbide para ser un servicio

un ente para la gestión para la tramitación y para la sobrefiscalización de prestaciones a día de hoy lanbide dedica ingentes esfuerzos a controlar a las personas perceptoras de prestaciones nosotros creemos que eso no es lo que tiene que ser un servicio público de empleo la introducción con calzador en nuestra opinión de la gestión de prestaciones como la rgi en lanbide

etcétera que se debe hacer en lanbide en el camino al empleo que es lo que no se está pudiendo hacer y es lo que nos gustaría que fuera capaz de hacer un servicio público en el que nosotros creemos profundamente pero que tiene que ser eficaz y ahora no está pudiendo serlo

con el modelo existente ha generado además problemas serios a miles de personas

y discrecionalidad situaciones que muchas veces han acabado en demandas contra lanbide y que suponen un lastre más para el trabajo que tiene que hacer el servicio respecto al empleo

o extinciones de un derecho esto es una afección grave a la ciudadanía que tiene derecho a esas prestaciones pero además esto repercute en el trabajo que tiene que hacer lanbide respecto

a ofrecer a la ciudadanía vasca empleo de calidad con condiciones dignas al tiempo que acompaña a las que no acceden al mismo a una formación que garantice el desarrollo y el reciclaje si fuera

y para eso señora vicelehendakari hay que darle una buena vuelta a lanbide porque ahora mismo no se está pudiendo dedicar a hacer eso
tal y como se ha gestionado y se ha diseñado lanbide eskerrik asko hernández jauna mendia andrea zurea da hitza

la preocupación que manifiesta el señor hernández y creo que es una

desde el gobierno pero con los grupos de esta cámara todos queremos que el sistema público de empleo vasco lanbide sea una herramienta útil para conseguir el objetivo que todos queremos que es emplear a la gente que tenga buenos empleos y por lo tanto darle la formación adecuada que demanda el sector

diaria de la renta de garantía de ingresos a lo que se va a sumar también la gestión del ingreso mínimo vital obliga a hacer cambios en la organización de lanbide como le decía

estamos avanzando de la mano de los jefes de servicio en un análisis de dónde se encuentran las cargas de trabajo máximas los cuellos de botella en lanbide para empezar a actuar desde el inicio del próximo año porque es verdad que con la reforma de la renta de garantía de ingresos y con la ley de empleo que aprobaremos en esta legislatura conseguiremos también

una herramienta mucho más útil y que cumpla los objetivos para los que se creó pero no vamos a esperar hasta entonces y vamos a comenzar a actuar desde el principio y sobre todo también tenemos un proyecto estratégico para lanbide que pasa por la digitalización totalmente alineado

que profundicen en su digitalización porque eso facilitará los procesos y facilitará el trabajo de los

más adecuada y más ajustada de los trabajadores que vayan a buscar un empleo a lanbide con ese proyecto de digitalización conseguiremos aprovecharnos

la inteligencia artificial aplicada a los servicios públicos de empleo por esa línea vamos a trabajar

con todas las medidas con la colaboración del parlamento en la aprobación de estas leyes tan importantes conseguiremos sentar las bases de un buen servicio vasco de empleo que tratará de llegar a ese objetivo que todos compartimos que es subir el índice de activación laboral muchas gracias

ikuspegitik ere egitea el conflicto

temporal no es patrimonio de la empresa privada y yo creo que a veces parecen compartir la misma cultura laboral

fraudulenta y abusiva se disponen de plantillas flexibles y vulnerables a través de contrataciones temporales para el desempeño de trabajos permanentes y estructurales y como he dicho la administración pública lejos de ser un ejemplo en el respeto a la estabilidad en el empleo se ha convertido en la empleadora con las tasas de temporalidad más alta y el problema no es nuevo ni desconocido para los que estamos y las que estamos aquí y ya al final de la anterior legislatura euskal herria bildu

rechazada en la que pretendimos aportar nuestra propuesta de respuesta a esta situación

infringen la directiva europea para la prevención de abuso en la contratación temporal

pero como ya decíamos en la anterior legislatura y esto lo explicaba muy bien también mi compañera rebeka ubera la tasa de eventualidad del empleo público en la capv no es fruto de la casualidad

consecuencia de un modelo de contratación que se ha aplicado durante décadas quizás consecuencia de la decisión que buscaba un sistema público más delgado más flexible más dependiente y más privatizado con la consecuencia de una planificación errónea

o la incapacidad de dar respuesta mediante la negociación a los retos y problemas

presenta o probablemente todos estos factores juntos a la vez enplegu publikoan dugun egoera oso gordina da sailburu andrea legegintzaldi

junto con otras que más adelante desgranaré ayudarán

que ha abocado a una tasa de temporalidad elevada todo ello ha de acometerse además

gure buruari tranpak ez egiteko un margen de temporalidad en la administración por lo tanto

pues responde a causas no estructurales que la contratación temporal nos ayuda a afrontar a necesidades organizativas coyunturales que de otra forma tendrían una solución muy difícil

creo que es bueno que entendamos que tendremos que dar por bueno un porcentaje de interinidad asumible

sostenible y adecuada a la demanda ciudadana planteada en cada momento esan dudan bezala bestelakoa da interinoen kontzeptua hau da

zuzendu beharreko erronka dela en todo caso

que esta situación ha sido generada en gran parte por causas exógenas algunas tan claras y manifiestas como las limitaciones impuestas desde normas presupuestarias estatales

a las limitaciones que en dos mil diez autorizaban exclusivamente

a un quince por ciento de la tasa de reposición a un diez por ciento en dos mil once y fueron prohibidas entre los ejercicios dos mil doce y dos mil quince

la normativa presupuestaria básica permitió a las administraciones públicas acometer procesos de estabilización en plazas estructurales vacantes y dotadas presupuestariamente

eta gainera lanpostu berriak aldatzeko eta definitzeko balioko du quiero dejar claro por tanto que para planificar las necesidades de la administración vasca y para configurar nuevas fórmulas de gestión en los procesos selectivos de empleo público

y en ello estamos dos que desaparezcan aquellas normas de carácter básico que actúan como freno para una adecuada y ágil cobertura de vacantes en definitiva

para reducir las tasas de temporalidad sino que se habrán de plantear diferentes medidas insertadas en las diferentes políticas y herramientas de empleo público

con sus procesos de concurso de traslados previos procesos de gestión y dimensionamiento de las plantillas

como nuevos planes de igualdad programas de prevención y promoción de la salud con el foco puesto en generar contextos de trabajos saludables

un elenco de medidas múltiple que implementadas de forma ordenada nos permitirán reducir las tasas de temporalidad a un porcentaje que sea asumible por todos

y sobre todo que siga haciendo de nuestra administración una organización con vocación de servicio público de personas que atienden a personas

por lo tanto nuestra posición es la defensa de la regulación de un proceso de consolidación de empleo público donde sus condiciones antigüedad qué tipos de pruebas

por la administración con los sindicatos con dos objetivos claros uno bajar las tasas de temporalidad

y dos que el colectivo de personas con contratos temporales interinas a las que se dirigen estos procesos puedan consolidar su empleo y no lo pierdan

y para ello para euskal herria bildu eta amaituko dut la negociación colectiva en el ámbito público debe de tener un protagonismo principal en la solución e implementar

sino también para revisar los sistemas de contratación vigente y adoptar las medidas necesarias que eviten que la solución que

de acuerdo con el calendario legislativo nos hemos comprometido a la remisión a esta cámara de dos proyectos de ley la ley de empleo público y la ley de cuerpos y escalas de la administración de la comunidad autónoma este parlamento

tan decisivas para la racionalización organización y eficiencia del servicio público y la atención ciudadana y por supuesto

todos los grupos parlamentarios van a tener la oportunidad de posicionarse con propuestas concretas hacía usted alusión en su interpelación al proyecto de ley de cuerpos y escalas

es crucial para poder afrontar la aprobación y realización de un proceso de consolidación a través de la convocatoria de una oferta de empleo público en dos mil veintiuno y precisamente por ello hemos procurado remitirla con la mayor agilidad posible a la cámara de cara a su pronta aprobación efectivamente

relativas a la consolidación del empleo temporal en las administraciones públicas vascas desde algunos sindicatos se han tachado estas disposiciones como insuficientes e insatisfactorias

también hemos podido escuchar críticas a las mismas por justamente lo contrario amparar un marco demasiado generoso y favorable al personal interino y contrario a la constitución

que el proyecto cuenta con todos los informes jurídicos preceptivos y que desde el departamento consideramos que el proyecto tiene el aval jurídico suficiente para su adecuada tramitación

para poder detallar y compartir con todos los grupos parlamentarios los pormenores de este proyecto dena den ez nuke bukatu nahi izango

los datos siguen siendo escandaloso en los cinco últimos años se han repartido a cincuenta y ocho millónes de euros

para ello se han utilizado diferentes subvenciones lehiatu ardoa lehiatu berria lehiatu promoción

las cuentas son claras más de la mitad de esos cincuenta y ocho millónes lo reciben dieciséis empresas no pymes han cobrado treinta y tres millónes de euros pero una de las dieciséis

el dieciocho por ciento de las subvenciones repito ella sola casi la quinta parte de las ayudas en manos de una sola empresa cvne bodegas

empresas reciben el sesenta y dos por ciento del total casi treinta y seis

vuelvo a repetir cinco empresas el sesenta y dos por ciento y ochenta bodegas familiares y pequeñas bodegas el siete por ciento

me parece muy preocupante y más si tenemos en cuenta que algunas de esas empresas no pymes quieren además la uva a precio de saldo que no respetan los costes de producción y que pagan por debajo de ellos

decía que desde este departamento consideramos a las bodegas familiares y a las bodegas pequeñas en rioja alavesa las consideradas como pymes e incluso micropymes como un instrumento esencial para dinamizar la vida y la economía en rioja alavesa y para articular territorialmente

en los últimos cinco años decía usted se han concedido ayudas por valor de cincuenta y ocho millónes de euros a las bodegas de rioja alavesa y de esos cincuenta y ocho millónes el cuarenta y dos por ciento ha ido destinado a bodegas con categoría pyme

del producto la mejora de la calidad de nuestro vino la mejora de la venta en el exterior de la promoción y de la apuesta en mercados diferentes de este vino y especialmente las beneficiadas precisamente de esa salida al exterior han sido las pequeñas bodegas las grandes ya estaban en el exterior

dos mil veinte durante este ejercicio que hemos hecho como usted decía

exterior a misiones comerciales a asistencia a ferias catálogos y presentaciones donde precisamente las bodegas pequeñas y las familiares son las que más espacio tienen porque son las que más necesidad tienen las grandes ya lo hacen per se donde más puede ayudar el gobierno es en este tipo de actuaciones se han destinado quinientos mil euros el programa ardoa

de mejora en bodega desde luego han alcanzado también un valor importante y ha llegado a las estructuras más pequeñas a las micropymes aquellas a las que precisamente las fuentes de financiación más habituales son un poco más difíciles de llegar por tanto

a las más pequeñas el programa sendotu destinado a que

tener unos prestamos de naturaleza especial garantizados por financiación del propio departamento para la realización de inversiones en bodegas

que hay que recordar que es un programa que viene

pero cada comunidad autónoma tiene capacidad de priorizar uno de los criterios y en euskadi precisamente el que se prioriza es el de apoyar las bodegas pyme por tanto ahí también se hace un esfuerzo especial usted decía también baita ere

almacenamiento cuando viene ocm es la que es común para todas las comunidades autónomas por venir

se otorgan ayudas por casi dos millónes de euros también se ha puesto

comercial es decir para que esas pequeñas sobre todo pequeñas empresas pequeñas bodegas y bodegas familiares puedan canalizar su distribución

ochenta empresas ochenta empresas pequeñas y familiares también en ese sentido en el ejercicio de dos mil veinte hemos puesto en marcha la iniciativa

para el apoyo al sector de las bebidas bajo la marca promocional

en algunos canales de distribución de una cierta relevancia para qué para posicionar ese tipo de vino un poquito especial

con esa marca qué significa eso y hacia dónde vamos a ir también en el año dos mil veintiuno y lo verán ustedes y me quiero centrar en este especialmente se va a fomentar se va a promocionar el vino

elaborado con al menos ochenta y cinco por ciento de uva producida en rioja alavesa de uva de txakoli

de cebada de euskadi de manzana de euskadi por tanto ochenta y cinco por ciento de uva local algo que usted también me preguntaba por tanto

hincapié no solamente en promoción sino en el posicionar ese tipo de

con una trazabilidad que va a estar garantizada por el canal de así de todas maneras seguimos pensando que tenemos que asegurar el mantenimiento de la capacidad operativa de nuestras empresas

la mayor cantidad el mayor volumen de vino almacenado durante este tiempo

en elementos de innovación sobre todo comercial para esas pequeñas bodegas apostar también por la digitalización del sector y en este caso para las empresas del sector

y desde luego además de esas ayudas que ya hemos establecido el pasado año continuar profundizando en algunas de ellas dedicadas sobre todo y quiero insistir en la comercialización

que ha comentado quizá por remordimientos de conciencia al ver cuántas bodegas se quedaban fuera de las anteriores pero el problema estructural continúa

las bodegas como ha comentado se dividen en cuatro grupos

estas últimas tienen menos de diez trabajadores y estas son las realmente pequeñas y son a su vez mayoría

ya he dicho llevan un siete por ciento las micropymes que es de las que estoy hablando

fomentar el desarrollo rural mejorar la renta agraria y mejorar el valor de las materias primas en este caso de la uva pero vemos que no lo estamos consiguiendo

y si las perdemos perdemos el modo de vida de los pueblos perdemos los pueblos en definitiva villabuena eskuernaga por ejemplo es una localidad con el mayor número de bodegas por habitante a nivel mundial

apenas hay nacimientos se ha cerrado la escuela de educación infantil local porque no hay niños la población está envejeciendo enormemente no hay relevo no es la única en rioja alavesa en la comarca doce de los quince municipios están perdiendo población samaniego trece coma cuarenta y ocho por ciento villabuena nueve coma cuarenta y uno por ciento

cuántas veces se va a retrasar cuántas veces se les va a decir que no utilizando cualquier excusa

la tramitación administrativa correspondiente se ha realizado la primera parte de la tramitación se han recibido las alegaciones se han analizado y en este momento se ha paralizado el proceso para qué para pedir y se le ha pedido a los representantes de abra que son quienes hicieron la solicitud

lo que hemos dicho siempre desde el primer momento es que vamos a hacer la tramitación administrativa adecuada para que llegue a los lugares correspondientes para que tengamos un expediente robusto

si hubiéramos tratado de poner obstáculos hubiéramos dicho que no en el primer momento y no ha sido así

adecuada y robusta y lo quiero repetir de nuevo desde aquí eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako hamargarren puntua galdera iker casanova

tengo un problema que a veces al preparar los temas se me ocurren chistes malos relacionados con la cuestión cuando hablamos de aeronáutica por ejemplo digo hay no sé cuántos empleos en el aire no luego lo quito porque creo que es casi humor negro ahora se me ocurre que usted acaba de pasar con el tema del vino un mal trago pero

han trabajado y siguen trabajando por la investigación por la tecnología por la innovación

empresas competitivas y productos competitivos porque lo hacen todos los días piense en ellos porque quizá a quienes esté molestando

desde luego sinceramente participo en muchas ocasiones con usted en multitud de debates de estas características

desde luego poniendo en entredicho la actitud y la actividad de muchas de esas personas de muchas de esas instituciones si usted cree que la

desde luego está usted un poco desenfocado en cualquier caso qué va a hacer el gobierno lo que ha hecho analizar en profundidad qué es lo que ocurre dónde están nuestras debilidades dónde están nuestras fortalezas y tratar de mejorar aquel lugar donde estamos más débiles y podemos mejorar

kelvin un físico y matemático británico y decía lo que no se define no se puede mejorar

lo que no se mide perdón no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre por tanto definir cómo lo dice europa medir evaluar
y actuar esa es nuestra forma de hacer eskerrik asko tapia andrea casanova jauna zurea da hitza

a los profesionales de un sector determinado si critico al consejero de salud me estoy metiendo con los profesionales de osakidetza y si critico al consejero de educación me estoy metiendo con los profesores de educación no señora tapia

la política de su gobierno y usted ha hablado de mediciones sí de mediciones vamos a hablar de mediciones estas son las mediciones no sé si verá desde ahí los colores de las líneas la línea azul la línea azul es la evolución

empieza una sostenida línea descendente que se estabiliza sin ninguna tendencia de recuperación la línea verde que es la europea nos supera claramente con una tendencia al alza

que es la que es prácticamente paralela a la línea vasca es la línea del estado español esta es la medición y aquí no estoy poniendo en cuestión el trabajo de nadie estoy poniendo en cuestión

y no las estoy poniendo en cuestión yo las están poniendo en cuestión los resultados usted salió a valorar rápidamente un dato del instituto nacional de estadística y yo no sé si ha valorado el dato del eustat no lo he visto igual lo ha hecho y yo no lo he visto

en cabeza dentro del estado español y usted da una entrevista en la que se felicita de ello

con que la comunidad autónoma vasca es la que menos ha incrementado por encima de la rioja únicamente su inversión

en el último año la que menos si vamos a compararnos con los países sabemos que estamos a la cola de los países desarrollados si vamos a hablar de innovación

sobre cuatro en innovación por tanto no se enfade conmigo señora tapia enfádese con la realidad y usted creo que ha dado la clave la clave de por qué está sucediendo todo esto cuando he dicho que el gobierno vasco va a seguir trabajando como hasta ahora evidentemente

hacer siempre lo mismo y pretender un resultado distinto es un síntoma de locura los resultados son los que cuestionan su política no mi intervención y no trate de desviar

que lleva fracasando en los resultados en los últimos años y por tanto es usted la que tiene que liderar un cambio de rumbo y de timón

jauna solamente dos cosas una los resultados de investigación no se miden única y exclusivamente por los recursos que se disponen el gobierno lleva incrementando durante bastantes años más del cinco por ciento todos los años a partir de ahora el seis por ciento otras administraciones también lo hacen pero la parte privada es la que más invierte ahora bien la que más debe invertir también hay otros resultados que hay que medir donde también tenemos

hay que evaluar todos y cada uno de esos elementos hay que mejorar todos y cada uno de esos elementos y desde luego el gobierno los evalúa los analiza y pone medidas para desde su punto de vista mejorar incrementar recursos incrementar recursos en personas incrementar la innovación donde realmente tenemos un lugar donde hay mucho que mejorar y continuar avanzando

usted huye hacia adelante en esta carrera que sabe que tiene perdida tiene en contra la geología

ya llegó a la conclusión de que solo se podía extraer esto viablemente haciendo fracking la permeabilidad del yacimiento es baja y para explotar yacimiento se sabe que habría que perforar un montón de pozos

ya dijo que no se consideraba la formación balmaseda un objetivo potencial por su baja tasa orgánica de carbono tiene en contra los antecedentes

nunca a pesar de haberla prometido mucho y no es a la tercera va la vencida san antoniomenos uno aulestimenos uno cormoránmenos uno izarramenos uno izarraminus bata armentiamenos uno el cotomenos uno

viuramenos uno viuramenos trece once y no es una alineación futbolística es la lista

en los treinta y siete años de vida y el balance de esta aventura ha sido la pérdida de mucho más de cien millónes de euros en el acumulado

porque usted se empeña en darles nuestro dinero para que siga despilfarrándolo

en el lugar escogido no se pueden hacer actividades extractivas

y tiene en contra a gasteiz no tiene licencia social

para allanar el camino con atajos en la ordenación urbanística y tiene en contra la incertidumbre judicial los permisos de investigación son de seis años más tres de prórroga usted lo sabe y están siendo estirados de manera dudosa cuando menos el tema está judicializado y estamos a la espera de una sentencia de la audiencia nacional que puede anular no ya solo el pozo sino el proyecto y si fuera poco tiene en contra la futura legislación la ley de transición energética y cambio climático busca prohibir la exploración y la explotación de hidrocarburos y usted con todo en contra huye hacia adelante apoyando esto y no solo eso

de cinismo que la coloca al borde del negacionismo climático declara esta semana que este proyecto es parte del impulso a las renovables a las renovables no sé si se ha dado cuenta que desde hace no mucho usted también es responsable de las políticas climáticas de este gobierno

le está pidiendo prudencia la situación le pide que el esfuerzo público se centre exclusivamente en el despliegue renovable lo que haya en el subsuelo alavés

y puede seguir un poquito más porque ahora toca luchar con todo lo que tengamos contra el cambio climático y no tirar el dinero en pozos inútiles

de lanza de un proyecto que sabemos estéril pero que traería cientos de pozos

escenario puede insistir pero si lo hace le recuerdo que usted será la única responsable política y téngalo claro porque le vamos a pedir responsabilidades

señor otero para eso estamos en política para que nos pidan responsabilidades por lo que hacemos está claro gauza bat argi utzi nahi dizut cuando estamos hablando de cinismo vamos a aplicarnos un poquito el cuento porque cuando uno dice que es mejor traer el gas

miles de kilómetros y con un setenta por ciento más de emisiones de gases de efecto invernadero y está usted diciendo que está luchando contra el cambio climático pues igual un poquito de cinismo también verdad

la tecnología avanza a una velocidad como usted bien sabe y el señor casanova nos acaba de

explorar de una forma más detallada de una forma muchísimo mejor y desde luego más avanzada además en tercer lugar el avance de esas tecnologías hace que bueno seamos podamos ser más eficientes uno de los elementos que nos ayuda a que ese proyecto desde luego con las mayores garantías medioambientales y con las mayores garantías de eficiencia luego ambientalmente con todas las garantías

ambiental en este nuevo departamento no se preocupe usted razones económicas que usted aduce evidentemente hay que analizarlas por eso estamos hablando de explorar

lo que hay en ese subsuelo es explotable o no pero usted me habla de que ya lo dijo no sé qué

hay que evaluar señor casanova pero hay que evaluar con datos y hay que evaluarlo de forma fehaciente no con unos análisis sin ningún tipo de contraste luego

zurea da hitza gracias señora presidenta señor consejero

a sacar este tema y esto no es seguramente casualidad sino que es un síntoma de que tenemos un problema de con el tema de la innovación

y soy yo ahora el que me dirijo a usted una vez más reiterándole mis disculpas

al periodo de gestión de su antecesora y también sobre un tema que sé que no entra directamente dentro de sus competencias porque de hecho no entra directamente dentro de las competencias de una consejería es decir está a caballo entre

etcétera y esto es una muestra de que tenemos un problema con este asunto yo creo

bueno es verdad que en este momento tenemos algunos datos concretos que nos hacen pensar o que nos hacen traer el tema aquí por ejemplo el dato del gasto público que se acaba de mencionar también

se ha visto reducido el cero coma cinco por ciento desde dos mil doce fecha en la que ocupó el cargo el señor urkullu como lehendakari al cero coma cuarenta y cinco en bi mila hemezortzi existen otros estudios

muy rigurosos al respecto los habrán revisado todos y habrá datos diferentes pero todos ellos coinciden

y esto repito vuelve a poner de manifiesto vuelve a poner encima de la mesa que tenemos un problema que tenemos un gran problema con innovación en este país

escuchar ahora en sus palabras que se va a corregir y que se va a invertir y que se va a cambiar la dirección pero supongo que

pero el dato está ahí y no podemos obviarlo y lo preocupante no es el dato en sí mismo lo preocupante es que marca una tendencia que no es precisamente al alza y no hace falta que me extienda en la importancia de la innovación y más en estos momentos mi pregunta por lo tanto es muy concreta

y qué piensa hacer para corregirlo eskerrik asko gil jauna

gil jauna tal como usted sabe el panel europeo de indicadores de innovación

según la capacidad en la innovación en cuatro grupos países líderes en innovación países con alta innovación países con innovación moderada o países con baja innovación euskadi ha consolidado la posición

con alta innovación esto significa o implica obtener una media superior al noventa y cinco por ciento de la registrada por los países de la unión europea

en el año dos mil diecinueve cuando en el año dos mil doce

únicamente representaba el noventa y uno coma nueve por ciento también yo creo que estaremos de acuerdo que la financiación pública

la única variable en este sentido y también y utilizando una serie de informes pero los mismos que ha utilizado usted y en este caso el eustat del pasado veinte de noviembre donde cabe resaltarse

es decir el uno coma ochenta y seis por ciento sobre el pib en dos mil diecinueve mientras que en españa alcanzó únicamente el uno coma veinticuatro muchas gracias

gil jauna zurea da hitza no sé si lo que estamos diciendo es que como estamos entre los países con más alta innovación no debe preocuparnos

señor consejero yo creo que negando la evidencia no avanzamos que la inversión pública haya disminuido desde dos mil doce desde mi punto de vista significa dos cosas o puede significar dos cosas dos posibles hipótesis una de ellas es

no cree en la innovación puesto que cada vez se invierte menos o piensa

quizá por eso se ha nombrado a la señora cristina uriarte como comisionada de innovación quizá por eso

el peso la ubicación y el protagonismo que debiera quizá por eso entre el dos mil diez y el dos mil diecisiete tenemos el número de patentes como dijimos hace

ha bajado un cuarenta por ciento la segunda opción la segunda hipótesis que se me ocurre es que el gobierno esté haciendo una gestión a corto plazo

que es lo correcto digo porque es cierto que la innovación casi nunca produce

pero claro es que el gobierno nos está contando desde hace muchos años

cuando en realidad lo que estamos viendo es que en aquellos temas en los que la inversión es a largo plazo

espero que dentro de diez años las personas que estén aquí no puedan hacer esta misma pregunta gracias

muchas gracias por su pregunta como le he indicado en mi primera intervención

alcanzó un total de mil cuatrocientos ochenta y uno coma cuatro millónes de euros en la comunidad autónoma de euskadi

cincuenta y ocho millónes más de euros que el año anterior es decir un cuatro coma uno por ciento de incremento afianzando

y que posibilita alcanzar en el año dos mil diecinueve un nuevo máximo en la serie histórica de gasto desde el punto de vista del empleo supone casi

uno coma ocho por ciento más que el año anterior asimismo el personal investigador a dedicación plena aumentó más que la media en concreto un dos coma siete por ciento hasta las trece mil quinientos veinte personas la apuesta estratégica

es la que mayor incremento señala un seis coma tres por ciento más que el año anterior y los quinientos coma ocho millónes aportados representan ya

esta apuesta por la ciencia es una inversión rentable

en el retorno per cápita del programa europeo horizonte dos mil veinte con casi ciento sesenta millónes de euros conseguidos en dos mil diecinueve

se eleva a los seiscientos noventa millónes de euros y con respecto a la implicación de este gobierno que usted a la que usted me requería

donde continuaremos reforzándonos con el compromiso de esta legislatura de incrementar un seis por ciento de media anual las inversiones en

en el ámbito científico y universitario y este es nuestro compromiso

el aumento de un seis por ciento anual en esta legislatura muchas gracias eskerrik asko bildarratz jauna gai zerrendako hamahirugarren puntua galdera

gracias señora presidenta señor martínez zatón en una pregunta oral es difícil responder a una pregunta tan general como la que me plantea

la crisis que estamos padeciendo con la pandemia es evidente que la crisis del covid diecinueve está golpeando duramente en nuestro modo de vida poniendo

y nos está recordando que ante desafíos de esta envergadura son imprescindibles las respuestas de emergencia pero la base para resistir

de políticas y servicios sólidos por supuesto en sanidad pero también en vivienda y esta es la principal valoración que le puedo hacer teniendo en cuenta la respuesta que desde nuestro departamento estamos realizando a las necesidades sociales creadas en esta pandemia

el objetivo era pues decir que sí que tenemos política de vivienda comparativamente mejor que otras comunidades pero comparativamente con por ejemplo con europa pues tenemos bastantes déficits todavía tenemos cincuenta y cinco mil personas demandantes ahora mismo en etxebide tenemos un aumento de los desahucios de alquiler tenemos una burbuja de alquiler todavía

o de mil en bilbao y tenemos además según los datos de vivienda vacía gestionable

vacías tres mil de ellas en bilbao y mil en donosti pero al mismo tiempo

un decreto del derecho subjetivo sin aprobar un decreto de la vivienda vacía sin aprobar

varias veces en la pasada legislatura aprobó calendarios para esos decretos que han sido incumplidos por parte del gobierno y además somos la única comunidad autónoma que mantiene una política fiscal que nos cuesta trescientos setenta y cinco millónes de euros a todos los ciudadanos y ciudadanas

y le pregunto si se imagina usted esos trescientos setenta y cinco millónes de euros que nos cuesta el premio a la compra de vivienda si lo podríamos destinar al departamento de vivienda en política de alquiler para llegar a esas cincuenta y cinco mil personas y además que están en estos momentos demandando

pero además mis compañeros y compañeras de podemos pactaron con ustedes cinco millónes de euros en política de vivienda en los presupuestos del año dos mil veinte

comunitarias era un paso más por supuesto que no era la solución definitiva era un paso más en la política de vivienda ayer

eso eso no se ha aplicado sino que ustedes de forma unilateral lo que han hecho es destinarlo a ayudas para las personas

motivada por el covid que estamos de acuerdo con esas ayudas pero nos sorprende que se detraiga de política pública de vivienda esos cinco millónes de euros cuando al mismo tiempo estamos viendo cincuenta millónes de euros por ejemplo

de donosti cinco millónes de euros respecto a cincuenta millónes de euros y lo último que le quería preguntar respecto a esta materia seguramente tendremos más tiempo es que en su primera comparecencia en este parlamento

para nuestro caso para euskadi como sabe el gobierno de españa a través del ministerio de transporte y de la vicepresidencia segunda va a promover la nueva ley de vivienda en el que va a estar introducida

y como es evidente por ejemplo bilbao y donosti están dentro de ello el objetivo es proteger a los inquilinos y evitar la especulación en este sentido me gustaría preguntarle al señor arriola como consejero socialista y de vivienda del gobierno vasco

en el desarrollo de la futura ley de vivienda la regulación de los precios del alquiler del mercado privado también en euskadi eskerrik asko eskerrik asko

gracias señora presidenta señor martínez respondiendo a su pregunta efectivamente

han agravado la situación precaria de muchas personas en el ámbito de la vivienda por eso además de replicar las medidas dispuestas por el gobierno central en materia de alquileres y desahucios

del pago de las viviendas a las personas arrendatarias de viviendas protegidas afectadas

o por la caída de sus ingresos y en abril articulamos también ayudas en el mismo sentido para el pago de los alquileres en el mercado libre durante seis meses

efectivamente estas medidas no estaban incluidas en el presupuesto de origen del año veinte ha habido que articularlas y para articularlas ha habido ha habido hemos tenido necesidad de hacer

una emergencia que era necesaria acometer en base a las capacidades que teníamos en el primer caso los hogares beneficiarios

en el caso del alquiler libre a fecha dos de diciembre las personas que han recibido ayudas

le puedo anunciar que estamos ultimando una orden que extenderá en dos mil veintiuno la aplicación de estas ayudas

mientras persistan los efectos de la pandemia en el ámbito local la demanda que estamos atendiendo ha sido inferior a la que pensábamos y la que presupuestamos

de un colchón social que ha amortiguado el impacto quiero recordar que

la prestación complementaria de vivienda según datos del diecinueve a las que sumamos

receptoras de ayudas de emergencia social para el pago del alquiler seiscientos setenta y dos de la prestación económica de vivienda

todas estas ayudas han supuesto ochenta y ocho coma cinco millónes de euros si tenemos en cuenta además que

de vivienda pública de alquiler pagan rentas muy inferiores a las del mercado resulta que en euskadi sin contar con los perceptores de ayudas municipales para el pago del alquiler

de las políticas de vivienda en alquiler por supuesto es importante contener la subida del precio de los arrendamientos y seguimos trabajando en ello

pero siendo conscientes de que la herramienta más efectiva es disponer de un parque público en alquiler suficiente
y en eso seguiremos trabajando eskerrik asko arriola jauna

barrio jauna zurea da hitza muchas gracias

señora consejera consejeros señorías bien pensamos que este momento sanitario de salud que estamos viviendo y la crisis y los afectados y las afectadas por la misma pues merecen un momento de reflexión

dentro del ámbito de lo profesional o de lo técnico o de lo científico en relación con la asistencia médica especializada a muchas personas

interpelación porque pensamos que es un buen momento para plantear sobre todo pero también para tomar decisiones definitivas y positivas en relación con el papel de unos profesionales muy específicos los profesionales de geriatría de gerontología que se involucren

sanitaria en la red pública de salud en nuestros hospitales en nuestros centros de salud hoy se demuestran imprescindibles esas técnicas médicas especializadas orientadas fundamentalmente a los mayores a los pacientes mayores

esenciales se están demostrando esenciales esas técnicas especializadas de apoyo de asistencia de tratamiento a las personas mayores además

imprescindibles como especializadas demostrándose día a día que su presencia

declaraciones ha habido congresos ha habido artículos científicos ha habido pronunciamientos de las sociedades de todo tipo nosotros en el país vasco hay una sociedad ejemplar de geriatría gerontología zahartzaroa una sociedad

desde luego también y hay otras participa en los congresos o la sociedad española de geriatría y esas reclamaciones y las conclusiones de sus trabajos y de su actividad en relación

la presencia en los hospitales en los centros de salud de geriatras como especialistas

la cronicidad su tratamiento su seguimiento etcétera

que hay que implementar servicios de geriatría en el servicio vasco de salud hay además muchos especialistas pero hay dos especialistas que deben de abordar la cronicidad los médicos de atención primaria los médicos de familia y los geriatras yo creo que cada día está más claro que

es imprescindible es necesaria y los será sin duda como ya lo es en muchas partes

decidida de los geriatras dentro de los ámbitos públicos de asistencia sanitaria ha tenido

este análisis de esta situación de la involucración de los geriatras y de la inclusión de los geriatras y especialistas dentro de la red pública ha tenido

con interpelaciones con análisis por parte del departamento de salud nosotros recordamos una iniciativa importante en dos mil nueve

no sé si la firmó pero bueno el partido nacionalista vasco el partido socialista nuestro grupo parlamentario aralar es decir una enmienda de transacción una moción muy interesante muy importante

esa expectativa el parlamento vasco instaba al departamento de salud y consumo del gobierno vasco y esto estaba negociado en aquel momento a incorporar especialistas de geriatría en la red de osakidetza allá donde se considere más idónea y oportuna su función

a cuidados de enfermos crónicos o sea había una voluntad clara

lo que se planteaba también y lo que planteaban también los grupos parlamentarios todos los que he leído antes y también se hablaba en aquel momento de que el parlamento vasco instaba al departamento de sanidad y consumo del gobierno vasco a facilitar las condiciones necesarias para poder desarrollar y organizar la formación algo elemento fundamental la formación de especialidad de geriatría en la comunidad autónoma vasca bueno pues eso fue

entendiendo la importancia de esa cuestión nosotros queremos seguir entendiendo

que hay esa necesidad nos la han constatado responsables sanitarios anteriores a su responsabilidad en relación con esas cuestiones en respuestas además a preguntas parlamentarias sobre la participación de la geriatría de la gerontología en osakidetza ya se ha respondido anteriormente

se viene realizando una reflexión en aspectos relacionados con estas necesidades estas tipologías de puestos

teniendo en cuenta el impacto de las nuevas estructuras organizativas de las nuevas formas de gestión en la planificación de los recursos humanos ahora tenemos que decir de la nueva incidencia de la gravedad

su incidencia en la salud de las personas y desde luego ese objetivo y esa respuesta parlamentaria era la adecuación de los cuidados paliativos

de la pluripatología de la integración asistencial etcétera y es identificar en esas líneas de actuación y mejora que posibiliten mejor atención a estos pacientes estos pacientes mayores ese es el elemento fundamental

de geriatras en el sistema nacional de salud es una progresiva realidad debido a las

de su competencia a la hora de abordar todo lo relativo a la salud la existencia de las personas mayores y eso lo hemos visto en la última también relación de puestos en relación con la geriatría para la formación mir pues ahí está una buena cantidad ninguno de ellos desde luego parece ser

cada día el mayor protagonismo y cada día con mayor papel

nosotros entendemos que y por eso mismo iniciativa constructiva en relación con ver esa posibilidad de integración de los geriatras dentro del sistema público de salud de los hospitales de los centros de salud

hoy se hace más necesario que nunca después de la atención

hospitalaria en los centros de salud las personas mayores

médicos en la relación de profesionales que atienden esa franja de la población especialmente vulnerable además los mayores lo consideramos como importante

conocer los propósitos del gobierno en relación con la progresiva incorporación de las especialidades de geriatría gerontología

de salud esa es nuestra inquietud entendemos que efectuamos con esta interpelación una cuestión constructiva nos preocupamos por nuestros mayores por la salud

especialistas en ese tipo de tratamiento de la salud se incorporen al sistema público sanitario sería una garantía podremos ver la complejidad de cómo se vaya haciendo de cómo se vayan integrando pero entendemos esa necesidad y queremos compartirla con el gobierno

egun on el departamento de salud y se ha caracterizado siempre por su capacidad de adaptación e innovación

garantizando una asistencia de calidad a nuestra población en este sentido y en relación al tema de la geriatría

sobre envejecimiento cronicidad y dependencia entendiendo que nuestro contexto epidemiológico con un porcentaje elevado

exigía un modelo de atención basado en el y la paciente y su enfermedad y no tanto centrado exclusivamente en la resolución de problemas agudos

como un reto para nuestro sistema desde hace tiempo así cuando estamos hablando de cronicidad estamos hablando en gran parte de envejecimiento y de una serie de enfermedades crónicas que tienen en común características tales como el origen en muchos casos multifactorial habitualmente no suponen un riesgo inmediato para la vida de los y las pacientes aunque sí la esperanza de vida y condiciona una peor calidad de vida

precisan de cuidados y de atención de manera que con este planteamiento y desde hace tiempo se llevan trabajando diferentes aspectos con el objetivo de atención a esta parte tan importante de la población entre lo que podríamos mencionar

que permiten dar respuesta a las nuevas necesidades de la población como es el caso de la enfermera de enlace hospitalario o la enfermera de casos o la estratificación de la población que permite clasificar a los pacientes que a priori puedan requerir una mayor atención un mayor número de recursos con más de dieciséis mil pacientes identificados

son pacientes mayores y con una gran dependencia y fragilidad además

han ido evolucionando progresivamente ante esta nueva realidad garantizando tal y como hemos comentado una adaptación a esta situación social y epidemiológica sobre la cual en los últimos meses y en relación con la pandemia se ha puesto de manifiesto

la necesidad de tener que abordar de una manera más específica la atención al paciente mayor cabe destacar que en relación con esa adaptación

incluso pasos encaminados a poder incorporar la figura del o la geriatra dentro de nuestro ámbito asistencial

que desde hace cuatro años y con este objetivo de incorporar una visión más amplia hacia el paciente

una sección específica con la idea de proporcionar una asistencia integral e individualizada a la persona anciana incorporando para ello en su servicio

llegados a este punto desde el departamento de salud y desde

consideramos oportuno valorar la posibilidad de ir incorporando a especialistas de geriatría en nuestros equipos de cara a proporcionar

y dependencia de las personas mayores cambiando de esta manera el enfoque de la atención al paciente anciano estando más centrada en la funcionalidad y menos en la enfermedad asimismo si en relación con esta valoración se considerase oportuno osakidetza podrá cambiar su oferta asistencial

e incluso valorar la posibilidad de acreditar plazas de médico interno residente de geriatría eskerrik asko eskerrik asko

gracias presidenta y bueno gracias a la señora consejera por su respuesta me parece pues una buena respuesta y una buena noticia

sanidad la salud pública a la asistencia sanitaria ha dicho que el departamento de salud y el departamento antes de sanidad han tenido capacidad de adaptación efectivamente ahora se requiere esa adaptación la línea estratégica

tenemos que aplicar todos los recursos disponibles y desde luego la geriatría esa especialidad es recurso disponible

además como se ha dicho el papel de la atención a los mayores a la cronicidad al envejecimiento lo que es los problemas agudos trasciende el papel del geriatra lo que es la resolución solamente solamente quiero decir dar resolución de problemas algunos si no tiene una visión

la geriatra se involucra en un tratamiento más integral de ese envejecimiento y de la atención a la cronicidad ese es el elemento fundamental esos nuevos roles de los que usted también ha hablado cuáles serían

en lo que se refiere a la geriatría la gerontología es un rol ya clásico y es un rol ya consolidado que debe de ser nuevo en osakidetza no ha dicho que se han dado pasos

estamos hablando de un cambio importante bueno no sé si en lo estructural o en lo organizativo suponemos que no pero sí importante en la filosofía

del tratamiento al envejecimiento el tratamiento a las personas mayores por eso en ese sentido

o esa búsqueda de la necesidad de incorporar

distintas actividades asistenciales u hospitales o centros de salud bueno ahí se tratará de cuáles o ese es el elemento fundamental tenemos que saber para cuándo pregunto a la señora consejera porque luego eso tiene que tener vinculaciones dentro de la formación médica dentro de los que son los programas anuales mir para cuándo está previsto esa

de ese análisis de ese estudio para cuándo entiende ella que deben de estar hechas nosotros entendemos que urge después de haber

a los pacientes a la situación que estamos viviendo o sea que en ese sentido pues vista la disposición ahora lo que tenemos que poner sobre la mesa son los procedimientos

los expertos en geriatría las sociedades científicas siempre han hablado de que y siempre han aportado además ellos no es nuevo

sus intenciones y sus análisis de dónde de dónde actuar no desarrollar un programa de mejora de la atención a las personas mayores en los servicios de urgencias hospitalarias mejora de la atención

continuar con el desarrollo de las unidades de media estancia con criterios de planificación territorial crear redes de unidades multidisciplinares etcétera el tratamiento del alzheimer

la farmacología las prescripciones hay muchas cuestiones dentro de esa visión integral en la que pueden participar por eso yo vuelvo a decir que considero oportuno

que sea así ayudaremos al gobierno a que sea así y sí que me gustaría saber cuándo va a estar

en mi primera intervención he explicado que el plan de salud dos mil trece dos mil veinte

cronicidad y dependencia plan que deberemos evaluar a su término este mismo año

que incluirá como no puede ser de otra manera una atención

algo que va más allá de la mera incorporación de personas especializadas en geriatría o en gerontología en nuestros servicios asistenciales

del departamento para la presente legislatura el cuidado de la salud de las personas mayores tiene una presencia especial así

las desigualdades sociales y de género en la salud especialmente en una situación de crisis sanitaria y económica como la que vivimos el objetivo

para facilitar protección específica a quien más lo necesite personas mayores menores personas con alguna discapacidad personas

culturales y religiosas personas privadas de libertad

toda persona en situación de vulnerabilidad más en concreto

se va a impulsar un nuevo modelo integral de atención sociosanitario un plan de atención a la fragilidad de la persona mayor y otro dirigido a personas con

la creación en el departamento de salud de la nueva dirección de atención sociosanitaria es sin duda

como elementos fundamentales en el refuerzo de la estructura se establecerá un catálogo de recursos sociosanitarios y un modelo de financiación consensuado

se extenderá el servicio de teleasistencia a todas las personas mayores de ochenta años y se pondrá en marcha una línea específica de atención profesional a personas

para los próximos años queremos impulsar un nuevo modelo integral de atención sociosanitaria coordinando las redes primarias de asistencia sanitaria y social

para las personas mayores y dependientes que vivan en sus domicilios o en residencias la puesta en marcha de la historia electrónica sociosanitaria favorecerá una atención integrada entre todas las instituciones relacionadas

en el centro de toda actividad como ve no se trata solo de incorporar o no incorpora nuevas figuras sino

el pasado treinta de noviembre la dirección de la organización sanitaria integrada

decidió o mejor dicho comunicó la decisión del cierre del horario nocturno de doce de la noche a ocho de la mañana a partir del próximo uno de febrero del centro de atención continuada de deusto en bilbao a partir de esa fecha no va a haber servicio presencial

acudía al horario nocturno de este punto de atención continuada acudirá al hospital de basurto uno de los fines de este tipo de servicios lo hemos hablado en otras ocasiones es aliviar las cargas de urgencias hospitalarias

se consigue con este tipo de decisiones nuestra pregunta es sobre las razones que les llevan a la eliminación de este tipo de servicio creo no equivocarme

que usted seguramente me dará la misma respuesta que ya les han dado también a trabajadoras y trabajadores

que han expresado su disconformidad con la decisión en cualquier caso nos interesa la respuesta y nos interesa trasladarles que nos parece una mala decisión un paso atrás una pésima decisión y pedirles que den

en esta decisión nosotros pensamos que se trataba de un servicio necesario

pensamos que este tipo de servicios son útiles y por lo tanto nos parece que se debe revertir esta decisión dé marcha atrás en esta decisión reabran el servicio nocturno de atención presencial

precisar su afirmación al inicio de su intervención porque

la de sustituir la atención presencial en el punto de atención continuada de deusto desde las cero horas hasta las siete horas por la atención a domicilio y por la derivación de casos a las urgencias del hospital de basurto y que está justificada por la necesidad

de la forma más eficiente especialmente en una situación donde la pandemia causada por el covid está exigiendo todo el esfuerzo de nuestro sistema de salud

por un lado decidir si mantener el pac de deusto abierto es una necesidad esencial y la conclusión a la que han llegado las y los responsables de la gestión de la osi bilbao basurto junto con la dirección

es que no por otro lado garantizar que haya una alternativa cercana y eficaz para prestar la atención durante esas horas y la respuesta es que sí

con la misma perspectiva que hace un año entonces el esfuerzo de recursos profesionales para mantener abierto el pac de deusto desde medianoche a las ocho de la mañana

requieren un planteamiento distinto para dar respuesta a una situación distinta la atención a los y las vecinas de deusto está garantizada
que es lo realmente importante eskerrik asko eskerrik asko

reorganización parece que les sirve a ustedes para todo de estos cambios en los puntos de atención continuada hemos hablado en este parlamento de varios de ellos la reorganización ante una primera ola y una situación muy complicada para el sistema de salud público nosotros le hemos reconocido en todo momento

en una segunda ola no nos parece tan justificable como argumento para llevar a cabo este tipo de decisiones se lo hemos trasladado en alguna ocasión la reorganización como argumento antes de que llegara la pandemia también era esgrimida por el departamento nosotros no compartimos este tipo de decisiones

un servicio muy útil para la ciudadanía un servicio caracterizado por una cosa la fácil accesibilidad para las personas la mejor accesibilidad

sanitario ustedes están convirtiendo de esta manera la urgencia hospitalaria en una extensión de la consulta

es recorrer el camino inverso ustedes han argumentado también la baja utilización de servicios si no se potencia la atención primaria no se utiliza por último pensamos señor sagardui

no justifica el cierre de un servicio de urgencia nadie piensa en quitar a los bomberos porque no haya habido incendios forestales en los últimos tres años

este servicio nocturno en ese punto de atención continuada era importante es importante nosotros les pedimos que reconsideren esta decisión y si es por razón de la pandemia nosotros ya les décimos que pensamos que ya deberían haber estado preparados pero quisiéramos saber también qué planes tienen para cuando superemos esta situación besterik ez eskerrik asko

como bien saben los puntos de atención continuada ofrecen un servicio fuera

para aquellas personas que no han podido acudir a una cita en horario habitual o porque sufren alguna urgencia médica

desde el año dos mil quince el número de personas usuarias que acudieron al pac de deusto desde las ocho horas

hasta las ocho horas fue de media de cinco personas por noche dos mil veinte sigue siendo similar mantener el pac abierto desde medianoche hasta las ocho de la mañana exige la presencia durante todo ese tiempo de tres personas personal médico

tres personas ocho horas cada una de ellas para recibir a menos de cinco personas en un contexto diferente podemos entender que

el evitar a la ciudadanía que tenga que realizar un desplazamiento un poquito mayor por ejemplo hasta el hospital de basurto

en las actuales circunstancias es necesario priorizar la atención está

por un lado por el personal del propio pac de deusto que realiza atención a domicilio insisto realiza atención a domicilio sin necesidad de desplazamiento de las personas que lo requieran un servicio que no está en absoluto saturado

y por otro por las urgencias del hospital de basurto

ocho casos de urgencias menores además de disponer como es evidente

y capacidad suficiente para atender la demanda que pueda trasladarse desde deusto eskerrik asko eskerrik asko sagardui andrea

gracias presidenta de nuevo buenos días de nuevo a todos y a todas

bien el mundo de la cultura hemos hablado también de ello en esta cámara ante la situación de la pandemia

lo hicimos en la diputación permanente en aquellos meses de marzo

nos preocupamos después también en iniciativas parlamentarias lo hemos hecho también recientemente con la presentación de las líneas de gobierno con algunas iniciativas parlamentarias esa preocupación por el mundo por

de la cultura del arte de esas actividades afectadas desde luego esencialmente por la situación de la pandemia por la situación del covid hemeretzi y bueno

nos ha llamado la atención lógicamente por eso queremos analizar a través de esta interpelación esa situación

en respuestas a determinadas preguntas parlamentarias de este mismo parlamentario y también

y a la materialización de las ayudas a los profesionales de la cultura ayudas expuestas

y hemos visto según la información que nos manda el gobierno como para afectados de la crisis de covid diecinueve dentro de los profesionales de la cultura

el diecisiete por ciento de las ayudas extraordinarias establecidas para el sector fueron adjudicadas

profesionales a gentes de la cultura a las personas a los artistas

trescientos treinta solicitudes dos terceras partes han sido desestimadas doscientos diecinueve y solo ciento cuatro estimadas y tramitadas

fue muy llamativo en principio esta respuesta y el análisis de esta situación y luego

las ayudas eso quería decir que las ayudas esas ayudas establecidas no habían llegado a las personas no habían llegado a su fin al fin de neutralizar

se exigían por parte del mundo de la cultura incluso

si resultara poco en algún momento frente a las necesidades y la parálisis

en nuevas fórmulas pero finalmente nos encontramos con que se quedaron sin adjudicar

y medio de euros de aquella resolución de aquella convocatoria

está claro que bueno ha habido una nueva oleada

continúan las restricciones importantísima en las actividades culturales en la producción en las actividades artísticas continúan las restricciones en los espectáculos continúan las restricciones en las exposiciones no digamos nada de los conciertos los

alrededor de la cultura y de la necesidad de personas que participen de espectadores

de clientes de participantes visuales o activos o materiales en relación con toda esta actividad que despliega el mundo de la cultura el mundo del arte y

cómo serán los próximos meses para los creadores culturales artísticos empresas autónomos profesionales en el mundo del arte y de la cultura hay que decirle el señor consejero lo sabrá que hay desconcierto también inquietud intranquilidad preocupación en algunos casos enfado también

con la gestión de este tipo de ayudas planteadas y que se demostraban como necesarias no como decía antes la resolución de

de lanbide en relación con la convocatoria de ayudas a las personas profesionales de la cultura cuyas actividades han quedado

es la que aplicaba las cantidades de las que hemos hablado y la cuantía de la ayuda estaba

profesionales beneficiarias en los términos establecidos en el artículo tres como consecuencia de la declaración de estado de alarma etcétera etcétera y la cantidad

del listado de epígrafes iae y nos llama la atención la cuantificación

dos otros epígrafes sincronización montaje de películas

espectáculos fuera de establecimiento permanente uno de empresas de espectáculos cero pinturas tal tejidos plásticos en locales cero actores cine y teatro una

vinculados a la música vinculados al arte vinculados a la organización

al baile a la dirección artística

claro hay que saber un poco cómo estamos por qué esto es así qué se va a hacer si algo ha fallado podemos pensar pues han fallado en la gestión de las ayudas de las subvenciones

podido adjudicar más que el diecisiete por ciento de lo que estaba algo ha tenido que fallar

ha faltado información por ejemplo puede haber faltado información pero entendemos que las personas o los profesionales de la cultura estaban muy sensibilizados con que

sé faltan las ha habido requisitos imposibles o insuperables

denegaciones rigurosas o exageradas en relación con estas cuestiones bueno ahí está la situación de lo que hemos visto como una realidad en relación con la gestión de las ayudas y la poca adjudicación

porque estamos en una situación y seguimos la situación complicada de aquellos meses se sigue manteniendo cuáles cuáles son los propósitos del gobierno de cara a poner en marcha un plan de ayudas

por las restricciones y dificultades profesionales del referido sector visto además que ha habido dificultades en el acceso a estas ayudas por la cantidad de denegaciones

que se han visto establecidas por la resolución de las ayudas está claro que algo debe de pasar
y bueno pues el señor consejero nos informará eslerrik asko

que me haya planteado esta interpelación y en estos términos porque creo que nos ofrece la posibilidad de hablar de programas y planes de ayuda pero sobre todo nos da una oportunidad

a las medidas de apoyo al sector cultural que se han adoptado en diferentes ámbitos y desde diferentes instituciones desde el pasado mes de marzo

de las limitaciones y dificultades que han podido existir

empiezo por el final me pregunta por el propósito de las posibles

que se puedan implantar de cara a compensar de manera efectiva los perjuicios causados por restricciones y dificultades profesionales del referido sector

el parlamento en pleno aprobó una proposición no de ley consecuencia de una iniciativa del señor estarrona

reclamó a todas las instituciones públicas que se mantengan los presupuestos públicos que se destinan a la cultura instó al gobierno en primer lugar a que adopte las medidas necesarias para que se mantengan las actividades culturales y en segundo

y adopte perdón y adapte los criterios condiciones y obligaciones de las ayudas vigentes pues bien esos son

no de ley aprobada por este parlamento son los propósitos que van a guiar a nuestro departamento

en cualquier caso creo que son dos los principales retos que tenemos en estos momentos el primero y creo que incumbe a todas las instituciones públicas vascas es hacer todo lo posible para que la actividad cultural se pueda mantener

después del confinamiento general de primavera la mayor parte

a partir del día uno de junio en esta segunda ola

hemos conseguido que la mayor parte de la actividad cultural se haya mantenido y no se haya visto cerrada como otras actividades museos orquestas teatros salas de exposiciones centros culturales salas de cine bibliotecas archivos librerías

durante todos estos meses y permanecen abiertas y por lo tanto han podido desarrollar su actividad quedan

por ejemplo los locales hosteleros nocturnos que son también salas de concierto y diría que también los espectáculos itinerantes especialmente el teatro de calle en cualquier caso el mantenimiento de la programación cultural ha permitido a muchos agentes desarrollar su actividad profesional y a buena parte de la ciudadanía disfrutar de su tiempo libre y de la oferta cultural de forma tranquila y segura

municipios no sé lo que nos espera para los próximos meses hasta que seamos capaces de conseguir un equilibrio sostenible entre

en cualquier caso nuestro empeño será mantener abierta en la medida de lo posible la actividad cultural y ello va a depender como le he dicho antes de que todos instituciones profesionales y público mantengamos actitudes responsables y seguras y también va a exigir por parte de todas las instituciones un esfuerzo económico

en el caso del gobierno esto es especialmente importante porque mientras las ayudas de diputaciones y ayuntamientos se dirigen principalmente

y a la programación de contenidos de las convocatorias del gobierno dependen sobre todo las ayudas a la creación y a la producción cultural apoyos que son fundamentales para el mantenimiento de las estructuras y del tejido cultural profesional

hemos mantenido y resuelto todas las convocatorias en los ámbitos del fomento de la cultura y del patrimonio no ha habido ningún recorte y mediante estas convocatorias

quinientos sesenta y cinco proyectos unitarios independientes con una aportación económica total de más de dieciséis millónes de euros

por otro lado creo que es también importante que abordemos la definición de nuevas ayudas y las características que deben tener el año dos mil veinte ha tenido diferentes momentos

se estableció el confinamiento general y se suspendieron todas las actividades en aquel primer momento las instituciones se esforzaron en asegurar unos ingresos mínimos a todos los profesionales de la cultura y liquidez a empresas y a asociaciones profesionales culturales después vino el verano

desde que en agosto comenzó la segunda ola nos hemos esforzado en mantener la actividad

dirigidos a agentes privados de la cultura yo no quiero quitarme ninguna responsabilidad y estoy dispuesto a asumir lo que no hayamos hecho bien pero creo que en cualquier caso esta cuestión de las ayudas exige tener presente todas las ayudas que se pusieron en marcha y analizar las nuestras dentro de ese marco general

específicas dirigidas a algún sector en concreto ayudas directas que suponen un impacto en los ingresos o indirectas que afectan al balance económico creo que en cualquier caso sacar unas conclusiones generales nos puede dar una idea de dónde puede haber lagunas entre las ayudas oficiales ofrecidas

mi primera conclusión es la situación diferente en la que se han encontrado y desenvuelto los agentes públicos y los privados

en lo referente a la situación de los empleados en la actividad privada y su régimen de contratación

son las que han sido capaces de acceder más fácilmente a las ayudas mientras que las de menor estructura o más débiles son las que menos ayudas han recibido

o incluso las del ico son las estructuras empresariales prácticamente las únicas que las han solicitado mientras que las empresas de carácter asociativo autónomo en su mayor parte

en este caso también ha influido a la hora de plantearse la posibilidad de acogerse la exigencia normativa que exigía el mantenimiento en alta de los empleados durante los meses posteriores a la finalización

otra conclusión relevante es que como consecuencia de los criterios establecidos en las convocatorias o por las dificultades de los solicitantes para cumplirlos el número de solicitudes

muy inferior al previsto es también un dato destacable que prácticamente ninguna convocatoria haya agotado los recursos disponibles para conceder las ayudas en todas las instituciones

en este menor número de solicitudes presentadas y concedidas han podido influir diferentes factores

es posible que la información no haya llegado a todos los posibles destinatarios la mayor parte de las veces además de las comunicaciones realizadas a través de los medios de comunicación

se reforzó la comunicación a través de las asociaciones que representan a los diferentes profesionales la convocatoria más polémica ha sido la convocada por lanbide dirigida a asegurar algún ingreso a las personas autónomas o contratadas

que no hubiesen obtenido ningún ingreso en aquellos momentos el objetivo era asegurar algún ingreso solo se recibieron trescientos treinta solicitudes

euros sobre una bolsa de dos y medio millónes de las solicitudes presentadas se denegaron ciento cincuenta y tres por qué porque la mayor parte de los solicitantes ya habían cobrado otras prestaciones debían haber sido compatibles señor barrio

se denegaron otras diecinueve porque la actividad cultural no era su principal fuente de ingresos se debía haber hecho de otra manera señor barrio trece fueron denegadas por no encontrarse a los solicitantes dados de alta en las secciones correspondientes del iae

me ayuda a precisar señor barrio dónde empieza y termina la actividad cultural y quién debe ser considerado y quién no profesional de la cultura

deberíamos haber planteado un ingreso mínimo al margen de lanbide debíamos haber atendido criterios que contradijeran los que habitualmente se plantean en lanbide no son

agradeceré cualquier orientación que me quiera facilitar

sí gracias señora presidenta gracias consejero bueno está bien claro que las preguntas en el pleno de control las hago yo

los parlamentarios en relación con las cuestiones que salen con las actuaciones del gobierno con las ayudas que

es decir yo creo que estamos viendo que lo que ha ocurrido ha sido un poco una mezcla de esas

la calidad de los que se presentaban a las ayudas y el concepto desestimatorio pues eso lo tienen que analizar ustedes

vemos que sobre un plan de ayudas de dos millónes y medio de euros que solo se presenten tan pocas personas

estaba inquieto por su situación por la falta de recursos por la falta de actuaciones por la falta de capacidad de creación por muchas cuestiones por la falta de espectadores es decir es muy llamativo por eso es el planteamiento y el análisis

con esas cuestiones que yo planteaba antes con que algo ha fallado algo ha fallado

llegan las ayudas y se acaban inmediatamente es decir se saturan los teléfonos se saturan y aquí algo algo

y usted se hacía la pregunta también ha sido la información un defecto de información una información defectuosa pues eso es lo que tendrán

muy complicados en relación con el acceso no solamente los normales es decir efectivamente si son incompatibles las ayudas del ministerio de cultura con las ayudas de lanbide pues son incompatibles o sea y entonces

cualitativamente nos podrá decir algo porque hay muchos sectores involucrados en la cultura hay muchos sectores

artes escénicas en las creativas y entonces hay muchos y hay muchas personas que han acudido a los partidos políticos supongo que al suyo

no se gestiona se gestiona con mucha dificultad o sea que en ese sentido es como nosotros pensamos que dónde puede haber esas lagunas dónde pueden existir esas lagunas a las que usted se

también hay que decir que la dificultad de que son empresas pequeñas o la dificultad de que no se asocian suficientemente no el asunto es analizar más

generar y poder crear cauces de comunicación de información al sector muchas veces efectivamente las grandes empresas y las grandes empresas culturales las grandes empresas artísticas pues bueno tienen gestores saben

conocen el planteamiento de las ayudas efectivamente y se han puesto sobre la mesa

de la primera parte o de la primera oleada de la pandemia las importantes ayudas también que se dieron por parte del ministerio de cultura efectivamente y ahí estaban y son de agradecer pero en ese sentido

que de un planteamiento el diecisiete por ciento solamente se haya gestionado

tendremos que superar y eso es algo que queremos que superar porque no solamente en este momento sí usted ha hablado de que hay apertura de que de que pero

quedan locales lo que usted habla locales nocturnos de actuaciones musicales

pero lógicamente ahí están todos esos locales con actuaciones con público ligados a la hostelería pues han desaparecido muchos espectáculos que tienen que ver con la noche los cines

acaban tarde acaban a las doce muchas veces o sea los teatros incluso hay sesiones

y otro tipo de manifestaciones culturales festivales eso eso ha desaparecido o sea que entendemos que hay margen de actuación todavía para satisfacer al sector y para superar

en los requisitos imposibles en las denegaciones muy rigurosas

no yo y esperemos que de cara a esta

se pueda mejorar desde luego ese tratamiento al mundo cultural muchas gracias eskerrik asko barrio jauna erantzuteko zupiria jauna zurea da hitza

y mi obligación cuando tengo respuestas es dárselas pero podré pedirle la opinión

para responder algunas de las preguntas que de forma retórica he planteado es una evidencia

en esto de la política podemos responder alguna pregunta de esas que todavía no tienen respuesta

yo desde luego no estaba preparado y es muy probable que en muchas de mis decisiones haya errado

ante una situación tan complicada como esta pero insisto creo que el análisis de las ayudas debemos hacerlo dentro de un mapa general en el que estén

pero si establecemos una ayuda para garantizar un ingreso mínimo y hacemos nos olvidamos de todas de las ayudas

por el cese de la actividad nos olvidamos de los erte nos olvidamos de otras ayudas pues no vamos a hacer un buen análisis ni usted cuando me pregunta

junto a esas ayudas de lanbide se establecieron otras ayudas dirigidas

estas ayudas que contaban con un fondo de dos millónes de euros coincidieron en el tiempo con otras ayudas que fueron concedidas también o

álava y gipuzkoa estas sí eran compatibles porque así lo decidimos entre todos

a gastos de estructura de las empresas también en este caso hemos comprobado que con excepción de la diputación foral de bizkaia que lo planteó de otra manera los fondos destinados por el gobierno

y álava no se han agotado y aquí también pues surgen muchas preguntas no la necesidad exigimos

la reducción de ingresos pues esa justificación de ingresos se ha convertido en una dificultad la mayor parte de los solicitantes han recibido ayuda

y hemos comprobado que esa exigencia de demostrar el descenso de ingresos se ha convertido en dificultad no le voy a hacer la pregunta retórica de si lo teníamos que haber obviado

quiero decir que se ha hecho un esfuerzo y es muy probable por atender demandas que se nos estaban planteando en las diferentes reuniones y mesas en las que nos reuníamos pero es muy probable

hayamos reproducido algunas de las dificultades que existen en el sector o en algunas actividades del sector o en algunas profesiones vinculados al sector lo cual bueno pues efectivamente no hemos acertado y habrá que ver cómo le damos

cómo podemos plantear esta situación de otra manera en cualquier caso

a ayudas a los gastos de estructura de micropymes autónomos y asociaciones culturales en el caso del gobierno solo se gastó una cuarta parta cuatrocientos y pico mil euros qué hemos hecho con el resto porque en este caso sí hemos podido actuar sobre el resto bueno pues del resto

a la feria de durango para crear el programa zu non

en ocho localidades vascas y que treinta y dos grupos e intérpretes musicales

en ellos y hayan recibido una retribución por ello y con el restante millón y medio hemos concedido una subvención a euskal herriko musika bulegoa que ha asumido la responsabilidad de producir y organizar doscientos cincuenta conciertos y representaciones de música danza y teatro en diferentes localidades vascas

se le ha denominado beste bat y este circuito de artes en vivo ha permitido la contratación y actividad de los más destacados intérpretes de música

de salas de música vacías y la contratación de los servicios técnicos necesarios para la organización y la asistencia a estos conciertos espero que haya servido pues para que algunas personas hayan podido trabajar

el pasado treinta de octubre usted lamentó en este parlamento la emisión por parte de la e i te be

se limita a recoger el testimonio de una parte me parecieron unas palabras como las que el lehendakari dirigió esa misma mañana muy adecuadas que podían ir en la buena dirección pero desde nuestro grupo ya le exigimos yo le exigí también aquí personalmente que ya está bien y hay que pasar de las palabras a los hechos nosotros exigimos que la etb tiene que dejar de emitir contenidos que socaven las instituciones del estado que blanqueen el terrorismo

se pongan todos los medios para que se cumpla de una vez la ley de víctimas que obliga a los medios de comunicación social a que las expresiones contrarias a los valores democráticos

ni seis semanas mes y medio y de nuevo estamos aquí en la casilla de salida en el mismo lugar

basada en la agresión que sufrieron dos guardias civiles y sus parejas en la localidad navarra de alsasua

ha sido objeto de una serie por parte de la etb lejos de solidarizarse con las víctimas y condenar los hechos sucedidos la propia web de la etb ya anunciaba que

busca provocar la reflexión de los espectadores sobre lo sucedido y que se centrará sobre todo en los sentimientos de los encausados por si quedaban dudas de lo que significa esta declaración de intenciones

ha definido esta agresión como caso rocambolesco y ha señalado que los condenados son marionetas en manos de la justicia

que una emisión de la etb vuelva a estar más cerca de los sentimientos de los agresores
que de las víctimas muchas gracias eskerrik asko gordillo jauna

me cuesta mucho dar una opinión sobre una serie que aún no se ha emitido

todavía no he visto más que el primer capítulo no tengo una opinión sobre la serie

gordillo jauna zurea da hitza mire señor zupiria en la etb se lo digo por si no se ha dado cuenta

a teleherriko el primer capítulo de esta serie

es la misma del programa trescientos sesenta y es un motivo por el que le interpelé aquí en esta misma sede hace ya algún tiempo

en todo caso hay que reconocerles coherencia porque volvemos otra vez a lo mismo tienen una fijación enfermiza

como provocadora y autoritaria mientras que los agresores aparecen siempre retratados como pobres víctimas de una manipulación yo

el primer capítulo le recuerdo sus palabras del treinta de octubre estamos de nuevo ante una emisión de parte

se solidariza y contextualiza la actuación de los agresores aquí retratados como víctimas mientras que las verdaderas víctimas no reciben el mismo tratamiento ni aproximación por eso desde mi grupo

que se lleve a cabo este tipo de contextualización este tipo de series donde se coloca digo de nuevo a las víctimas como

y se hace con el dinero de todos por eso si quiere la etb y si quiere alguien realizar este tipo de contextualizaciones de lo que supuso este acto de agresión lo puede hacer con el relato de los hechos acreditado en la sentencia judicial y como decía al principio

de blanquear al terrorismo y mostrando sobre todo su apoyo a las víctimas muchas gracias eskerrik asko gordillo jauna zupiria jauna zurea da hitza

ha disfrutado de su derecho a hacer una crítica que yo respeto

la ley de creación del ente ha creado los órganos en los que se realiza el control de las emisiones de e i te be y de sus contenidos usted tiene mucho que decir en esos órganos

que vaya allí y lo haga y sobre el fondo de la cuestión

a las declaraciones que antes que yo hicieron el portavoz de gobierno

el quince de noviembre de dos mil dieciséis justo un mes más tarde de que se produjera la agresión el portavoz del gobierno textualmente dijo los hechos

graves y deben investigarse y esclarecerse

el portavoz mostró su sorpresa porque unos hechos que comenzaron siendo presentados por el ministerio y la propia guardia civil como delitos de odio

después la detención y la prisión preventiva de los acusados y finalmente la causa fuera llevada a la audiencia nacional donde fueron calificados y juzgados como delitos de terrorismo

al inicio del juicio dijo el portavoz desde el punto de vista jurídico hay disparidad de opiniones

consideran que deben juzgarse en la justicia ordinaria porque es un delito ordinario de alteración del orden público

y una sentencia justa y basada en la proporcionalidad y la racionalidad

que la justicia realizó una interpretación particularmente dura de este caso partiendo en un primer momento de su tipificación como terrorismo para después

pero manteniendo la dureza de las penas algo que al gobierno vasco le pareció desproporcionado teniendo en cuenta los hechos ocurridos eskerrik asko